como digo y quiero subrayar vivimos un ataque brutal a los derechos sociales básicos

austeridad y sacrificios para la mayoría y vaciamiento de recursos públicos corrupción tarjetas negras y alfombras rojas para una minoría

en el pleno de hace un año y casi ocho meses el ocho de marzo motivó que buena parte de las intervenciones hablaran sobre la penalización la doble penalización

a la vuelta al hogar e invisibiliza y resta valor o directamente ignora

todos y todas se conjuraban o nos conjurábamos en ese pleno para revertir drásticamente esa situación en qué ha variado en qué ha mejorado la situación de las mujeres en nada hoy las mujeres siguen cobrando menos que los hombres

siguen copando los trabajos temporales siguen teniendo mayor tasa de desempleo que los hombres y siguen teniendo una menor tasa de actividad

creo que sobran comentarios sobre la eficacia de los propósitos transformados en medidas que ese día y semanas posteriores como con el plan de empleo se anunciaron hoy igual que ayer la pobreza sigue teniendo mayoritariamente rostro de mujer o de mujeres para ser más exacto

vemos que la mitad de las mujeres pensionistas que perciben una pensión

vemos que el noventa y tres por ciento de las personas que perciben pensión de viudedad son mujeres

en el caso de las mujeres es de setecientos sesenta y nueve euros el setenta por ciento de las personas que perciben una pensión no contributiva son mujeres

con una pensión de trescientos cuarenta y seis euros mensuales no está de más tampoco recordar que el empleo a tiempo parcial la nueva modalidad de empleo que está creciendo como champiñones en nuestra sociedad es un empleo reservado para mayores mayoritariamente

a pesar de que el tribunal europeo reconoció que esta fórmula de cálculo de las pensiones era una medida discriminatoria hacia las mujeres el empleo a tiempo parcial

las mujeres siguen doblemente discriminadas doblemente castigadas nos encontrábamos también entonces con una radiografía dura extrema para cada vez más personas se nos hablaba de ciento setenta y ocho mil seis personas parados y paradas

se nos señalaba que el siete por ciento de las familias vascas tenía a todos sus miembros en desempleo que uno de cada cinco

euros que solo el seis por ciento de los contratos que se producían eran indefinidos que la tasa de pobreza en nuestro país era del once por ciento traducido a personas

más de doscientos mil vascos y vascas y que rondábamos ya las cien mil personas en situación de exclusión social y qué dice hoy la radiografía

en esa foto fija de hace un año y ocho meses veamos la radiografía de hoy nos arroja números

registradas y señalo lo de registradas me podrán decir quizás que en algo ha disminuido el paro que de ciento setenta y ocho mil a ciento setenta mil ochocientos veintidós hay un descenso entorno

pero ustedes y nosotros sabremos que nos estamos olvidando de todos los exiliados forzosos nos estaremos olvidando de todas las mujeres que han retornado al hogar y nos estaremos olvidando de toda la gente sobre todo de los parados de larga duración que tras la búsqueda desesperada de un empleo y no obtenerlo acuden o acaban por incluso

todo eso unido a una ineficacia en lanbide que todavía hoy no ha sido paliada ni reparada

pero en el caso de que se quiera sacar músculo con ese dato con ese leve descenso del paro no sé si desestacionalizado o no por este gobierno sí sé lo que dice el gobierno central

se puede sacar porque en esa progresión o con esa progresión de reducción del desempleo

aceptable o razonable para todos y para todas y esto creo que no es cuestión de ideologías si aceptamos el criterio del paro técnico como el paro soportable por una sociedad que quiere progresar

como digo no llegaríamos a una situación de paro técnico con esta progresión del descenso de desempleo hasta el dos mil cuarenta aproximadamente

si tienen que vivir del aire y de la nada hasta el dos mil cuarenta sin mentar el empleo que se está creando que es un empleo que reduce la calidad del mismo y que reduce los salarios de forma brutal la tasa de pobreza ha aumentado también desde hace un año y ocho meses hasta ahora hay quien la sitúa ya en torno al dieciséis por ciento la tasa de desempleo juvenil ha aumentado del cuarenta por ciento de hace un año y ocho meses hay quien lo sitúa ya en el cuarenta y dos coma siete por ciento y es el estudio más benévolo

del cuarenta y dos coma siete por ciento que dicen los datos más benévolos en la actualidad al cuarenta y seis por ciento que señalaba ayer cáritas elijan el que quieran porque cualquiera de los dos datos

esa es una foto tan poco estimulante como lo podía ser las imágenes de trainspotting de la película de danny boyle para los jóvenes no nos extraña que para eso otra voluntad que la de echar a correr y no parar y ante eso es normal que los jóvenes busquen fuera lo que aquí no somos capaces de ofrecerles esa exportación de talento que tan cínicamente

de nuestros gobernantes para hacer frente a sus necesidades necesidades por otra parte tan exigentes tan pretenciosas

porque señorías seamos sinceros quiénes de nosotros y nosotras alabaría aplaudiría daría por bueno o aceptaría un contrato precario parcial y mal

quiero creer que ninguno y ninguna de esta cámara lo haría mucho plan bolonia mucha formación profesional orientada a la inserción laboral mucha capacitación y a la vez

cada vez más insoportable e inservible muletilla de la generación mejor formada para tener que soportar

a la gran mayoría de nuestros jóvenes se nos señalaba también

que uno de cada cinco trabajadores y trabajadoras lo hacía por un salario inferior a mil euros hoy esa proporción es aún peor e igual que la devaluación general de los salarios

de los novecientos euros a día de hoy prácticamente el noventa y cinco por ciento de los contratos que se firman son temporales

viven en familias con falta severa de recursos la tasa de paro en la comunidad autónoma vasca solo es superada en europa por el reino de españa y por grecia

es cada vez también más alarmante sobre todo en sectores sociales como los mayores de cuarenta y cinco años ya que el cincuenta y cinco por ciento de las personas registradas

no cobran ningún tipo de prestación a la vista de la realidad o del diagnóstico podemos concluir o que el gobierno vasco erraba en el diagnóstico porque seguía políticas que mantenían

como sugieren informes que estamos conociendo estos días o no las ha llevado a la práctica no nos cabe concluir otra cosa viendo la demoledora la devastadora realidad

planteamos llevar acabo políticas decididas y eficientes y sin embargo vemos como el poder público como el gobierno vasco se pone de perfil o en el mejor de los casos

y los ejemplos a lo largo de esta legislatura que nos han acompañado no han sido pocos desde fagor edesa

todo eso mientras el gobierno vasco se limitaba únicamente a certificar anhelos buenas voluntades lo que le gustaría que no pasara

señalar que hay que respetar las leyes del mercado y que es el mercado el que determina unas normas que este gobierno no puede saltarse porque no es soberano se nos habla mientras tanto de la necesaria internacionalización y nosotras y nosotros lo que vemos

deslocalizaciones que ocultan y entierran dinero público otorgado para que se instalaran en forma de ayudas diferentes las fiscales las ayudas directas y las recalificaciones de suelo y que cuando se van solo engordan a quienes deciden irse a fabricar dejando en evidencia que su única lealtad y su única bandera es con el dinero se nos dice que trabajan arduamente para traer proyectos industriales y solo asistimos a una pérdida progresiva de nuestro tejido industrial desde que empezó la crisis

han cerrado dejando miles de personas en la calle y seguramente todos y todas estaremos de acuerdo en que no hay futuro para euskadi para euskal herria

de hacer desde la economía real un planteamiento de sociedad que contemple a todos y a todas pero esa es la realidad una realidad dura y mientras tanto hechos y palabras bien intencionadas de nula eficacia práctica las pequeñas y medianas empresas siguen ahogas porque no les conceden créditos y a la vez

se privatiza y al gobierno vasco parece no inquietarle en demasía el modelo cooperativo se debilita enormemente

y parece que nos seguimos preocupando más por captar empresas y ferias y eventos que por defender

pequeño y mediano y al pequeño comercio cuál es el modelo

queremos un país lleno de mercadonas y un país con muchos megaparks como el de ezkerraldea donde la precariedad laboral campa a sus anchas

en los bajos salarios y en la temporalidad creemos que eso nos acerca a una sociedad más justa lo que queremos para este país es una pena que no esté hoy aquí la señora tapia para poder preguntarle directamente cuál es su visión sobre su función en este gobierno si la de seguir fielmente y dócilmente los dictados de adam smith la de dejar hacer al mercado la de no intervenir en el mercado

en este pleno todos asentíamos cuando decíamos que había que intervenir en el mercado que el poder público tenía que ser capaz de corregir las desigualdades que el mercado provoca y sin embargo aquí lo que vemos es una fiel discípula de adam smith una teoría

bastante más arcaica y vetusta que la que algunos nos arrojan a la cabeza a otros por defender unas determinadas tesis políticas

generar condiciones dignas en las relaciones laborales a través del ejemplo que puede dar como empleador en la administración nos ofrece recortes amortizaciones

no entendemos su apuesta por equiparar las condiciones del mercado laboral entre lo público y lo privado devaluando las condiciones las condiciones laborales de lo público no nos queremos olvidar

mediante decretazo como el partido popular hace en madrid se cargó uno de los mayores consensos logrados en esta cámara las treinta y cinco horas laborales son ustedes los que en la práctica le han dado un tiro de gracia a una de las reivindicaciones más necesarias que no es otra que el reparto solidario del trabajo con derechos esa medida la de las treinta y cinco horas junto a la jubilación que nunca

y el contrato relevo a partir de los sesenta años son fundamentales para repartir el empleo sin embargo este gobierno emplea horas y horas

pero la realidad es tozuda y por mucho que nieguen que se está destruyendo empleo la realidad es que cada vez se pagan menos nóminas

y eso son recortes recortes que van en detrimento de la calidad del servicio recortes que afectan directamente a la ciudadanía hoy fuera buena parte de los sectores afectados por esos recortes en primera instancia en tanto y en cuanto que trabajadores y trabajadoras se lo están diciendo

y ante una realidad tan desigual y profundamente injusta el sistema de protección social del que gozamos o que tenemos que no es que sea importante sino que es directamente imprescindible

cómo debemos entender que la protección social la que garantiza dignidad para todos y todas con independencia de su origen o su estrato social se vea condicionada a los recursos disponibles

a pagar la deuda que no hemos generado u otras cuestiones no habíamos quedado en que todos y todas

estábamos de acuerdo en que era básico garantizar la cohesión social y evitar la fractura social no nos parecía inmoral meter eso en el debate político como señalaba el propio consejero por qué entonces

asko dago aldatzeko baina aldaketa egiteko esparrua da orain babes gabe direnentzako babesa eta prestazioa zabaltzea ayer mismo y hoy todos los periódicos ocupan de un informe

estamos deseosos de conocer la nueva encuesta que parece que ya existe que parece que hoy nos van a enseñar buen momento aunque algunos dispusieran de ella desde hace ya más tiempo y puedan ir soltando a cuenta gotas alguna otra cosa pero como digo

está afectada de riesgo de caer en la pobreza más de la mitad de los vascos y de las vascas de esta no se libra nadie prácticamente solo unos pocos nos dice que el sesenta y tres coma nueve

nos dice que hay más de un diez por ciento de hogares con la imposibilidad de seguir tratamientos médicos pautados y nos dice un seis por ciento de hogares que no pueden asegurar la alimentación al conjunto de las personas que viven en él esto no es la realidad de un país empobrecido

esta es la realidad del cuarto mundo que provoca este modelo económico y la estamos sufriendo la estamos viviendo día a día aquí en nuestro país en fin

no haya sido capaz de restaurar los recortes impuestos en la legislatura pasada en la rgi por el anterior gobierno por el gobierno del pse de la mano del partido popular

reforzar el sistema de protección social debería ser una prioridad la prioridad nos atrevemos a decir y ustedes mantienen los recortes y en algunos casos los acentúan es la oposición las que les viene indicando el camino pleno tras pleno que deberían seguir

donde resulta incomprensible la dejación de competencias que ustedes han decidido hacer dejando a los ayuntamientos

no quieren llegar se lo han indicado con las ayudas de conciliación cuál será el siguiente recorte al que tendremos que hacer frente desde las bancadas de la oposición para euska herria bildu la protección social no es caridad y no hay gasto público sino inversión en sociedad

a los embates de un capital que o no queremos o no sabemos o no podemos controlar ni dominar

que la mejor protección social es ofrecer un trabajo digno y reparto equitativo de la riqueza pero ya que ustedes señores del partido nacionalista vasco y señores del partido socialista decidieron hacer

o por lo menos al aplauso de únicamente confebask blindemos al menos y pese a eso el sistema

sacándose en un desayuno informativo una medida con una nueva trama impositiva alcanzar un objetivo concreto eso se hace teniendo un sistema fiscal equidistributivo y que obligue a pagar más al que más tiene para repartir mejor al que menos tiene

no le niego incluso su voluntad y ganas de intentar arreglar el problema lo que sí que tengo que censurar es su eficacia y su determinación final para que el problema se resuelva

es que hace un año y ocho meses teníamos una realidad y la que tenemos hoy es peor y probablemente usted en todo ese trayecto ha dicho cosas muy sensatas pero ha hecho pocas cosas prácticas

y es una pena que no podamos ver si finalmente la eficacia se iba a medir en la última fase de la legislatura y si sus medidas que tenían un marco temporal concreto iban a desarrollar

o su partido han decidido que su futuro que su cometido está en otro lugar y eso también

afecta al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas porque usted pilotaba una realidad y esa realidad se va a encontrar descabezada realmente sí señor aburto es increíble

pero que realmente año tras año sigamos asistiendo a cómo engordan las tasas de pobreza y de exclusión social en nuestro país esa es la triste realidad mientras tanto seguiremos hablando de lo bien que gestionamos las cosas de lo bien que gobernamos pero la realidad día a día en los barrios de bilbao que usted va a tener que conocer todavía de lo que seguros ya los conoce

decía pepe múgica que si llegaba al gobierno lo primero que haría sería invertir en educación lo segundo en educación y lo tercero en educación que esto

era y es fundamental para el desarrollo y avance de un pueblo si todos podemos llegar a compartir esto que la educación es la base de una sociedad en libertad y justa por qué se recorta por qué se devalúa la calidad del servicio por qué se permite que desde el estado nos impongan condiciones que debilitan nuestro modelo educativo por qué

por qué se aceptan modelos educativos segregacionistas y elitistas o se abre la puerta a la privatización de servicios sanitarios o asistenciales también está en sus manos

la sociedad vasca en primer término y la historia en segundo término elijamos qué papel queremos ocupar en ella todos y todas sabemos que

estaríamos avanzando de forma clara en el afianzamiento de una sociedad justa equilibrada sin pobreza y sin desempleo forzoso por ello desde euskal herria bildu trasladamos con claridad nuestra disposición a trabajar y colaborar con quién lo desee

realizables y posibles y en absoluto utópicos proponemos un acuerdo para garantizar que no haya recortes sociales y que la única prioridad el principal proyecto estratégico de nuestras acciones políticas sea mejorar las condiciones de vida de todos y todas con especial atención y prioridad a los y las más necesitadas

proponemos un acuerdo para realizar una reforma fiscal profunda y equidistributiva que haga que quién más tiene más aporte y que garantice recursos suficientes para la consolidación y blindaje de servicios públicos de calidad no inferiores a los que teníamos cuando la situación no era tan difícil porque lo que nadie entiende es que si la red de protección social que teníamos en el dos mil ocho cuando no había crisis era a veces incluso insuficiente con una realidad económica mejor ahora que la realidad económica es mucho más dura

proponemos un acuerdo para la creación de empleo un acuerdo que deje de lado el cemento como prioridad y las políticas especulativas como camino y se fije como objetivo como ambición y sin escatimar recursos el desarrollo humano social y económico del conjunto sin excluir a nadie

en el pequeño comercio en la agricultura y en los servicios públicos tenemos la ley de dependencia ahí para ver por qué modelo apostamos si por seguir

o por intentar generar las condiciones de cambio hacia uno nuevo mucho más justo proponemos un acuerdo finalmente que determine qué instrumentos necesitamos

para poder llevar a cabo las políticas que nuestros ciudadanos y ciudadanas nos reclaman una soberanía que nos permita determinar de qué marco laboral nos dotamos

de limitación e imposición y por supuesto para garantizar las pensiones las pensiones que suelen ser objeto arrojadizo de aquellos que defienden los fondos privados de pensiones debilitar el sistema público de pensiones y que junto con la lectura real de los datos de lanbide que nos dice que más de un treinta y cinco por ciento de demandantes o de perceptores de dichas ayudas ya son pensionistas nos hace dibujar un país que bien se podría recoger en la película de no es un país para viejos

siguiéndoles por la espalda y pese a este ejercicio de pragmatismo que acabamos de hacer hoy aquí con cuatro medidas concretas

nos exige que pongamos en pie es muy probable que nos vuelvan a tildar de utópicos que nos vuelvan a decir que es que no hay dinero y que por tanto es irrealizable

o a la deuda por citar un ejemplo podrían hacerse cosas pero todavía podría haber más

lo que todavía no vemos o no vemos con la claridad necesaria es voluntad política

la realidad se cambia con voluntad sí pero la primera de todas ellas es la voluntad política

no vamos a dejar de insistir en que para acabar con la pobreza con la precariedad laboral

existen alternativas que es nuestra responsabilidad buscar soluciones negarnos a gestionar la miseria

gracias presidenta buenos días a todas y a todos

lehendakari eh bildu nos plantea un debate monográfico sobre la estrategia integral a desarrollar

debate en el que deberemos exigir y exigimos al gobierno vasco que explique sus logros en todo este tiempo si es que ha habido alguno en relación

a favor de la creación del empleo por lo tanto pienso que este debate no es solamente importante para plantear al gobierno y exigir qué es lo que debe hacerse

al gobierno que dé cuentas sobre lo que ha hecho en todo este tiempo para acabar con la situación precaria de miles de ciudadanos sin duda

y el paro junto con la corrupción política que más preocupan y más importan en estos momentos a los ciudadanos y sin duda los que más directamente les afectan no podemos olvidar que la corrupción política tiene

en la situación económica del país y en la indignación creciente de la sociedad empleo y lucha contra la pobreza son asuntos que están íntimamente relacionados lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo con el gobierno vasco y con el gobierno de españa

cuando tanto a uno como al otro les hemos pedido en sede parlamentaria que pongan en marcha planes contra la pobreza y planes contra la pobreza infantil que la forma de luchar contra la pobreza bien sea la general la infantil o la energética es crear empleo

y mientras no se cree empleo cosas ambas que pueden tardar en llegar años y sí se puede y se debe hacer porque hay ciudadanos que no pueden esperar años

ya porque es ahora cuando la pobreza existe y los ciudadanos empobrecidos no pueden esperar años a que lleguen mejores los datos son demoledores la pobreza se está incrementando la desigualdad se está incrementando la precariedad laboral

y hay muchos ciudadanos que están viendo empeorada su situación y todo esto como consecuencia de las políticas que se han aplicado o que

venido aplicando en el pasado desde europa desde españa y desde euskadi

sino que son consecuencia de decisiones políticas concretas que deben cambiarse o corregirse cuanto antes decía que los datos son demoledores

elaborado por primera vez para euskadi el cuarenta y cinco coma tres por ciento de los vascos se encuentra en situación de vulnerabilidad social

y corren el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social si se prolongan las altas tasas de desempleo y de precariedad laboral y los recortes en los servicios públicos solo el treinta y ocho coma uno por ciento de la población vasca no se ha visto afectada

son el dieciséis coma siete por ciento de los ciudadanos es decir unas ciento personas el informe constata que el crecimiento económico no es suficiente para acabar con la crisis por lo que es necesario abordar un cambio en el modelo social para acabar situación de lo que no hay duda es de que los gobiernos deben aceptar que este es el problema más grave al que nos enfrentamos y que deben poner en marcha ya medidas concretas y planes específicos para atender a esa parte de la población con graves problemas económicos de que haya que seguir trabajando por la creación de empleo todos los días del año y más allá de que haya que mantener lo que ya tenemos o incluso fortalecerlo en concreto

protección social nosotros efectivamente propondremos perfeccionar pero para fortalecer el sistema vasco de protección social alerta este informe de que los hogares con más riesgo de caer en la pobreza si se prolonga la actual situación económica son aquellos donde viven

el perfil tipo de la pobreza en euskadi se corresponde con un varón de cincuenta y cinco años español o nacional de algún país de la unión europea con estudios bajos o muy bajos desempleado y sin ingresos el riesgo de exclusión social también se incrementa entre los jóvenes que no logran encontrar trabajo estable pese

y entre los mayores de cuarenta y cinco años que se han quedado sin trabajo y no ven la forma de conseguir uno nuevo los recortes de los servicios públicos han hecho según este informe que dos de cada diez personas se encuentren afectadas por la exclusión sanitaria en lo referido a la imposibilidad de seguir los tratamientos médicos prescritos

y de asegurar una alimentación suficiente y equilibrada en el seis coma uno por ciento de las familias la encuesta rebela también que cuatro de cada diez hogares vascos ha tenido

un ocho coma cuatro por ciento no puede asegurar la ingesta de proteínas tres veces por semana y el ocho coma nueve por ciento no puede adquirir alimentos para una dieta adecuada

y queda perfectamente evidenciado que la pobreza la desigualdad y la precariedad laboral de miles de ciudadanos son los principales problemas que existen a día de hoy

es posible que se nos diga que la situación de euskadi es mejor que la situación del resto de españa y siendo esto cierto tampoco podemos obviar que la situación en el país vasco ha empeorado

ha empeorado durante los dos últimos años ha empeorado en el último año y que en todo caso y a los datos señalados me remito hay miles de ciudadanos a los que atender de manera

que el resto de españa al fin y al cabo españa es el segundo país de la unión europea con por ejemplo más pobreza infantil solo superado por rumania por lo tanto en fin conocemos perfectamente los datos que afectan al conjunto del país y lo que le pedimos al consejero y lo que pedimos también a la portavoz del grupo nacionalistas vascos que no

que estamos mejor de lo que está el país que peor está de europa sino que piense efectivamente en la situación que nos encontramos en euskadi y la evolución que ha tenido esta situación en relación al crecimiento de la pobreza

del paro los datos vienen de atrás ya en julio de dos mil trece el departamento de empleo y políticas sociales del gobierno hizo públicos los datos recogidos en el primer estudio monográfico

infantil aquel informe ya detectaba que la pobreza infantil en euskadi afectaba entonces

la encuesta de pobreza y desigualdades sociales ya había rebelado que la crisis había duplicado el número de familias vascas sin recursos suficientes para atender a corto plazo sus gastos habituales ciento veinticuatro mil frente

los autores del trabajo presentado por el departamento alertaban ya en dicho informe de que estaba produciéndose un vuelco alarmante en dos

mientras que en dos mil doce solo suponían el doce por ciento y esto porque su sitio había sido ocupado por los niños en el mismo periodo de tiempo había pasado de ser

de entonces y los menores de treinta y cinco años ya superaba el cincuenta por ciento obviamente el sistema vasco de protección social supone un dique

en todo caso no está siendo suficiente y las cifras no llevan a engaño la situación es muy grave y se agrava año a año además

a todos los que la necesitan el veintiséis por ciento de las familias en situación de pobreza real no accedió a ella en el dos mil trece es por esto que

de octubre de dos mil trece es decir hace más de un año el parlamento exigió al gobierno vasco la elaboración y el impulso de un plan que recogiera las medidas necesarias para hacer frente a la pobreza

plan que no ha sido presentado en esta cámara se le daba un plazo al gobierno de cuatro meses para que pudiera presentar este plan de lucha contra la pobreza cuatro meses

lo ha presentado lo único que ha dicho es que tenemos un buen sistema de protección social nosotros volveremos a exigir la presentación de este

un año y el gobierno sigue sin presentar este plan además se ha producido en este último año un incremento de la pobreza energética en este sentido cabe recordar también que el veintisiete de febrero de este mismo año se aprobó a propuesta del grupo socialista una iniciativa en la que se instaba al gobierno a que en el ejercicio de capacidad de autogobierno que le asiste

que a ningún ciudadano se le pueda cortar la luz el agua o el gas

de no poder atender sus facturas en especial en las épocas de mayor demanda este mandato parlamentario también ha sido incumplido por parte

desproporcionado a la energía doméstica la pobreza energética aquella que padecen aquellas familias incapaces de mantener una temperatura adecuada en sus viviendas afectaba en euskadi en dos mil doce al cuatro por ciento de los hogares lo que se traducía

ya en dos mil trece esta cifra aumentó hasta alcanzar

afectados pediremos otra vez al gobierno que aborde esta cuestión y volveremos a pedir al gobierno que incremente

destinada a las ayudas de emergencia social tanto para este año como para el siguiente para que en el próximo año efectivamente se cubran las necesidades y la demanda

social es cuestión de voluntad política le digo al gobierno lo que le pude decir no hace demasiado al consejero de empleo y asuntos sociales es cuestión de voluntad política dinero

a la construcción de san mames diez millónes de euros para las obras de anoeta o catorce millónes de euros para el buesa arena proyectos que no eran ni son prioritarios

de las ayudas de emergencia social que cumplan con los requisitos legales establecidos cómo no lo va a haber

de voluntad política del mismo modo que hay voluntad política para incrementar las ayudas a la euskaldunización a la e i te be u otros gastos que no son en absoluto prioritarios

todas las solicitudes de ayudas de emergencia social que cumplan con los requisitos legales establecidos por tanto esto también se lo volveremos a exigir

y el gobierno es responsable directo un incremento de la pobreza un incremento de la pobreza infantil y un incremento de la pobreza energética además se ha producido un incremento de la desigualdad y un incremento de la precariedad laboral hay más gente que hace un año que lo está pasando muy mal y hay mucha gente que ya estaba mal hace un año y hoy está y el gobierno vasco mientras esto ocurre no ha presentado un plan contra la pobreza ni ha presentado un plan contra la pobreza infantil ni ha presentado un plan contra la pobreza energética

relativos a las ayudas de emergencia social todo esto se lo volveremos a pedir y le exigiremos además que perfeccione para fortalecerlo el sistema vasco social estos son los asuntos prioritarios que debe atender el gobierno vasco el paro se ha incrementado en euskadi

la cifra alcanza los ciento setenta mil ochocientos veintidós desempleados

que al inicio de la legislatura estamos peor que al inicio de la legislatura hay más parados hay más desempleo

un seis coma ochenta y tres por ciento más que en septiembre en octubre se formalizaron en el país vasco setenta y siete mil novecientos treinta contratos temporales y

contratos indefinidos en el conjunto de españa el noventa y cinco por ciento de los contratos que se firman son temporales en euskadi ocurre algo parecido predomina por tanto la temporalidad la precariedad

contratos muchos de estos datos demuestran que las últimas reformas laborales del gobierno de españa además de injustas han sido un auténtico fracaso así como las distintas decisiones de los distintos gobiernos seis de cada diez parados vascos lleva un año sin en empleo cuatro de cada diez parados vascos lleva dos años

tenemos una tasa de paro juvenil del cuarenta por ciento solo el nueve por ciento de los contratos nuevos que se firman son indefinidos

el veintidós por ciento de las familias numerosas tira de ahorros o se endeuda para acabar el mes y se consolida una nueva clase social personas que trabajan pero que no llegan a final de mes

los gastos básicos el veinticinco por ciento de los hogares es incapaz de afrontar los gastos o imprevistos todo esto dibuja un panorama insostenible económica y socialmente este gobierno no solamente ha sido incapaz de revertir la situación

de la paralización de las inversiones productivas y a través de los recortes sociales tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario o de las ayudas sociales

de las que está impulsando el gobierno de españa y de las que está impulsando también el gobierno vasco hay que hacer otras cosas por lo tanto para revertir la situación

el problema fundamental que tenemos a día de hoy los ciudadanos vascos el asunto sobre el que más esfuerzos debemos realizar los representantes de los ciudadanos creo que los representantes políticos debemos siempre tener como objetivo primordial garantizar y proteger el bienestar de los ciudadanos y por tanto en época de crisis como la actual tratar de impulsar las medidas necesarias para superar esta

o cumplir el objetivo de déficit esto no es superar la situación superar la situación es luchar y acabar con la pobreza la exclusión

contra el paro atender como merecen a los que menos tienen e implementar medidas que sirvan para incentivar la actividad económica y poder crear empleo estable y de calidad

y no existen soluciones mágicas pero es responsabilidad del gobierno hacer que esto sea posible y sino logra los resultados prometidos

en este pleno monográfico pedir cuentas al gobierno que explique la situación en la que nos encontramos que explique sus logros si es que ha habido algún logro y que explique

pero sobre todo qué objetivos han cumplido la puesta en marcha de todas esas medidas las decisiones en materia económica tomadas por parte del gobierno de españa

nos han perjudicado la decisión de impulsar recortes sociales sobre recortes sociales impulsar recortes en educación sanidad o dependencia o reducir la ayuda a la

contraproducentes las políticas de austeridad al límite son un verdadero disparate nosotros abogamos por la austeridad selectiva es decir

para destinar los recursos públicos a lo verdaderamente

salvaguardar el estado del bienestar y la cohesión social e incentivar la actividad económica ayudar a nuestras empresas en todo lo que sea posible sabiendo en todo caso que los poderes públicos pueden poner las condiciones pero que son en última instancia las empresas los empresarios y los emprendedores quienes terminan creando

sabiendo en todo caso que no vivimos en una isla y dar cuenta insisto de lo que se ha hecho en todo este tiempo que explique las medidas que se han tomado

para salir de esta situación nosotros no nos opondremos o nos opondremos mejor dicho nos opondremos a unos presupuestos que incluyan recortes sociales

la actividad económica y crear empleo digno estable y de calidad por tanto es al gobierno vasco al que corresponde presentar

los resultados obtenidos las medidas que se han puesto en marcha y las medidas o decisiones que va a tomar a partir del día de hoy este pleno monográfico por lo tanto

esperamos hoy que tanto el gobierno vasco como por cierto los partidos políticos que lo han sustentado en el último año expliquen a la ciudadanía

últimos meses qué expliquen si efectivamente esos acuerdos que se anunciaron como fundamentales para cambiar la realidad han tenido efecto o realmente no han servido

en fin lo logros obtenidos por los diferentes planes de empleo

firmado con el grupo socialista que lo explique que expliquen cuáles han sido

alcanzados respecto al mercado de trabajo el principal problema que sigue sufriendo el mercado de trabajo español y también el vasco

la fragmentación entre empleo indefinido y un empleo temporal desprotegido esto ha hecho que más del noventa por ciento de los nuevos empleos sean los jóvenes quedan atrapados en la trampa de la temporalidad sin acceder nunca al empleo fijo lo cual obviamente afecta a su protección por desempleo sus pensiones

no entraré en mayores análisis pero ni la limitación de contratos temporales ni el contrato para la formación ni el contrato por aprendizaje ni el nuevo contrato para pymes y autónomos

solución a la situación del desempleo en españa y en euskadi tal como venimos comprobando

el mercado de trabajo en profundidad todos los nuevos contratos deberían ser indefinidos y los temporales suprimidos excepto para sustitución de bajas y empleos temporales justificados habría que implantar progresivamente el derecho a conservar las indemnizaciones por despido acumuladas

facilitando así el cambio voluntario de puesto de trabajo conservando el derecho a las indemnizaciones acumuladas habría que desarrollar la contratación a tiempo parcial

digna y competitiva habría que promover horarios más racionales semejantes a los del resto de europa que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar

de sistemas de teletrabajo mejorar las políticas activas de empleo basadas en la formación de desempleados establecer sistemas de evaluación de la calidad y eficacia de los cursos de formación para los desempleados hacer que lanbide cumpla la labor para la que surgió

y que efectivamente se ponga orden en el servicio vasco habría que incrementar el control de la incapacidad laboral para evitar el absentismo injustificado

laboral habría que exigir la estricta vigilancia de la política de prevención de riesgos laborales para reducir la siniestralidad

habría que fomentar las acciones tendentes a incentiva la movilidad geográfica

habría que promover programas de consumo responsable potenciar la utilización de energías más baratas y menos contaminantes habría que apoyar

para las familias habría que eliminar los numerosos obstáculos y trámites injustificados que aún subsisten para la creación de empresas habría que diseñar

el modelo productivo sino que proporcione las condiciones favorables para que los empresarios hacerlo habría que incentivar fiscalmente la internacionalización de las pymes en fin hay que impulsar la creación de nuevas empresas fomentar

conquistar nuevos mercados o aumentar la cuota en los existentes mejorar nuestro sistema educativo desde la primaria hasta la secundaria la formación profesional

reinvertir emprender reformular los programas existentes y actualizarlos internacionalizarse internacionalizarse tanto las empresas como los recursos humanos y los propios estudiantes

la biotecnología la nanotecnología en conclusión y para terminar para salir de la crisis es indispensable abandonar la senda

y por contraproducentes impulsar políticas para el crecimiento económico y destinar nuestros recursos a lo importante salvaguardar el estado del bienestar las políticas sociales la sanidad la educación y la cohesión

se trata de priorizar porque cuando se nos recuerda por parte del gobierno y por parte de todos los gobiernos que no hay dinero suficiente habrá que responder que nunca hay dinero suficiente para todo pero que siempre tiene que haber dinero suficiente para lo importante y en euskadi sigue existiendo a día de hoy mucho gasto improductivo que hay que a la mínima expresión para destinar los recursos públicos a la ciudadanía para salvaguardar las prioridades que asisten al conjunto de los ciudadanos y desde luego aquí también cabe señalar

el entramado institucional vasco que hay que reformar la ley de territorios históricos que hay que reducir las duplicidades las ineficiencias y las desigualdades producidas por nuestro caduco entramado institucional que es el momento de hacerlo porque ya han pasado demasiados años y sigue sin hacerse y los momentos de crisis también tienen que aprovecharse

reducir drásticamente el sector público societario absolutamente inflado que padecemos y reducir la grasa de la administración y obviamente

contra el fraude fiscal todas estas medidas para liberar recursos que puedan ser destinados a los ciudadanos que peor lo están pasando ampliar y fortalecer el estado del bienestar y el sistema vasco de protección social incluidas las ayudas de emergencia

los recursos son escasos debemos marcarnos prioridades abandonar obras socialmente innecesarias o económicamente

y por infraestructuras que sirvan para mejorar la vida de la gente e incentivar la actividad económica

de nuestras empresas necesitamos medidas de estimulo y financiación de la actividad productiva especialmente entre las pymes no hay soluciones mágicas pero algunas cosas evidentemente se pueden hacer por tanto tenemos desempleo desempleo juvenil desempleo de larga duración incremento de la precariedad laboral incremento de la desigualdad incremento de la pobreza vascos que tienen que irse al exterior

y desahucios resolver estos problemas o al menos mitigarlos debería ser prioritario para este gobierno esta es por lo tanto su principal tarea

a los ciudadanos de la crisis atender a los que peor lo están pasando impulsar políticas y medidas y reformas para hacer todo esto posible en lugar de impulsar recortes sociales solucionar los problemas de la gente y si no puede hacerlo dar cuenta de ello

hoy mismo han pasado ya dos meses desde el inicio de la legislatura señor consejero señor lehendakari dónde están los resultados

sailburuok legebiltzarkideok la pobreza y la exclusión social son graves situaciones que afectan al bienestar y a la dignidad de las personas el aumento de los niveles de pobreza

más duros de la crisis simultáneamente se han incrementado los niveles de desigualdad y ha disminuido la renta de las familias pobreziari

el impacto de la crisis económica y sus consecuencias

conocíamos datos del informe específico sobre la exclusión y el desarrollo social del país vasco elaborado por la fundación fomento de estudios sociales y sociología aplicada foessa que apunta que el dieciséis coma siete por ciento de los ciudadanos

están en riesgo severo de exclusión y pobreza

hemos conocido un dato que entendemos que debe de levar a la reflexión de este gobierno

intensa crece en euskadi más rápido que en otras comunidades autónomas pobrezia eta prekarietate handien sufritzen dutenak

en este sentido la situación de crisis y sus consecuencias no ha afectado a todas las personas por igual sino que ha golpeado especialmente a quienes ya estaban

la pobreza se ha agravado en los grupos especialmente vulnerables que ya la sufrían los pobres son más pobres y las formas severas o intensas de pobreza se han

al riesgo de situaciones de pobreza dadas las características de su dependencia haur pobreziari buruz hitz egitea pobreziaz orokorrean

analisiaren ikuspuntutik el informe al que anteriormente hemos hecho referencia también pone de manifiesto esta realidad alertando de que los hogares con más riesgo de caer en la pobreza si se prolonga la actual crisis son aquellos donde viven hijos menores

haciendo referencia a los datos de la incidencia de la pobreza infantil en euskadi

de pobreza de mantenimiento lo que representa el once coma ocho por ciento de esa población

es decir el diez coma cinco viven en una situación de ausencia de bienestar

umeen bizitzeko baldintzetan eta etorkizunean izan dezakeen eragina todo ello no impide reconocer la necesidad de desarrollar políticas

tanto en lo que se refiere a reducir la incidencia de la pobreza entre las familias con hijos

como a reducir el impacto que tiene en las condiciones de vida y en las perspectivas de futuro de los niños y niñas que se encuentran en esa situación el apoyo a las familias

lo que significa que ahora más que nunca las políticas familiares constituyen una inversión ineludible para garantizar la cohesión social y prevenir la pobreza

a la decisión de este gobierno de recortar las ayudas a las familias en concreto las ayudas a la conciliación

también hay que considerar el deterioro en la calidad o el equilibrio de la dieta alimentaria

el ararteko en el informe de la oficina de la infancia y la adolescencia de dos mil trece señala que aunque ni desde los servicios sociales ni desde el sistema sanitario educativo se han detectado un incremento sustancial y alarmante de esta situaciones desde la presentación del informe en el dos mil trece ya en ese informe se apuntaba que dieciséis mil niños y niñas podrían encontrarse en esa situación

tal y como también apuntaba el ararteko estar atentos a la evolución de las necesidades de alimentación con el objeto de articular en su caso las medidas pertinentes para paliar su impacto

la edad es otro condicionante importante en la medición de la pobreza de hecho

y hablando del perfil tipo de la pobreza en euskadi se corresponde con un varón con una mujer de mediana edad con estudios bajos desempleado y sin ingresos

y entre los mayores de cuarenta y cinco años que se han quedado sin trabajo y no ven la posibilidad de encontrar uno nuevo pese a tener una dilatada experiencia profesional

y la probabilidad de estar en riesgo de pobreza depende de relación con el mercado laboral por lo tanto la prioridad absoluta de este gobierno debe de ser la creación de empleo en una comunidad autónoma en la comunidad autónoma del país vasco en donde estamos viendo

es inferior al resto de comunidades autónomas la pobreza en su conjunto y la pobreza infantil tiene consecuencias directas en el bienestar y la calidad de vida de sus miembros

y desempleo en la edad adulta pobrezia orokorrean eta haur pobrezia

es cierto que el sistema vasco de protección social ha contribuido y de hecho contribuye a paliar y reducir las situaciones de exclusión garantizando unos niveles de

sin embargo a la vez es necesario modificar aspectos sustanciales del mismo

garantizar la inclusión en el sistema de las personas que realmente lo necesitan así como reforzar todas las acciones dirigidas a la reinserción sociolaboral de las personas en estas situaciones el sistema a la vez tiene que tener alertas para detectar a las personas en situaciones de especial dificultad o riesgo de exclusión

más vulnerables como las personas sin hogar las personas

las personas mayores las personas en situación de dependencia la población inmigrante las víctimas de violencia de género particularmente mujeres y menores

los poderes públicos están obligados a adoptar medidas concretas en aquellos factores que inciden directamente

en la educación porque la educación tiene una conexión directa con el bienestar y la cohesión social la educación y la formación constituyen un pilar básico en la construcción

desenvolvimiento de toda sociedad en la vivienda también hay que incidir porque la vivienda es un aspecto esencial en la vida de las personas y las familias

hay que destacar y no podemos olvidar los problemas que están teniendo un número elevado de familias para mantener sus viviendas en buena medida debido a las dificultades crecientes

esto ha llevado a un aumento en el número y en el nivel de ejecuciones hipotecarias la percepción de la salud también es una cuestión importante de las personas

que es peor o tienen una percepción de que tienen peor salud que las personas ocupadas lo cual es claramente el reflejo del impacto socio sanitario del desempleo sobre las personas que lo sufren el empleo el empleo es el pilar central de la inclusión y su opuesto por tanto el desempleo

aunque se ha comenzado a crear empleo y a revertir la situación que teníamos hace unos años

sigue alcanzando cifras muy elevadas y es muy preocupante la tasa de paro que afecta a los jóvenes o a los parados

otra de las cuestiones que también hay que destacar y que no podemos obviar es el incremento del número de hogares en donde todos los miembros activos están en paro

y la exclusión social así como paliar este tipo de situaciones ha de estar en los primeros puestos de la agenda política de cualquier gobierno y también de este gobierno la estrategia europea dos mil veinte establece entre sus objetivos el de disminuir antes de dos mil veinte

dado que son múltiples los factores que determinan la pobreza es necesario desarrollar políticas integradas

personas en riesgo de pobreza o que ya están en situación de pobreza la atención a los grupos vulnerables debe de ser una prioridad para este gobierno

la educación o la vivienda en relación al sistema vasco de protección social garantizar un sistema de prestaciones justo y solidario que permita un vida digna a aquellas personas que están en una situación de necesidad es una de las cuestiones

y entendemos que este gobierno ha tomado una serie de decisiones

como es no complementar las ayudas de emergencia social que son competencia del gobierno vasco y que tienen que complementar los ayuntamientos que están resultando absolutamente insuficiente y recortar como ya he dicho anteriormente las ayudas a la conciliación con el

de soporte y de paliar las situaciones de necesidad

y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la ley por parte de lanbide era una oportunidad para conectar las ayudas sociales también a la empleabilidad

no nos podemos conformar con que las personas reciban un subsidio no nos podemos conformar con ello las personas que están dentro del sistema de protección social se merecen tener una oportunidad y tenemos que poner todo nuestro empeño en dársela

debe ser la no cronificación de las personas en el sistema de ayudas sociales y su inserción laboral en este sentido

que estamos continuamente constatando que este gobierno tiene que subsanar para que este servicio pueda cumplir las funciones que tiene atribuidas en relación con la gestión de las ayudas sociales

que el servicio vasco de empleo tenga una tasa de intermediación del dos coma uno por ciento

cifra muy inferior a las que tenía el propio inem este gobierno

persiguiendo la inclusión sociolaboral a través del empleo de las personas más vulnerables con una especial atención a las personas con hijos menores de edad en situación o riesgo de exclusión

específicas emitidas por el consejo de la unión europea adoptar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o exclusión social

con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado de trabajo y mejorando el objetivo la adecuación y eficiencia de las medidas de apoyo incluidos servicios de ayuda

específica dirigida a los estados miembros hay que hacer especial hincapié en las mejoras del empleo de las personas de baja calificación

a los grupos de población menos cualificados especialmente los jóvenes por ello hay que promover la inclusión activa

hay que desarrollar mercados laborales inclusivos para los colectivos con especiales dificultades de inserción socio laboral promoviendo itinerarios integrales de inserción

la actual coyuntura de crisis económica está claro que genera nuevos desafíos en materia de prevención de pobreza y exclusión social y en este sentido se ha constatado la persistencia de algunos perfiles de población como grupos de riesgo de pobreza y exclusión

que tienen que incluirse entre los grupos de riesgo la labor de los servicios sociales en líneas generales obviamente hay muchas cuestiones susceptibles de ser mejorada puede ser positiva pero no obstante a nuestro entender la valoración en términos de inclusión laboral y las personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social presenta márgenes de mejora y ahí tiene un papel fundamental y esencial lanbide servicio vasco de empleo con las competencias funciones que tiene

no reciben los servicios de empleo con la intensidad o especifidad necesarias

perpetuándose por tanto su situación de vulnerabilidad es necesario como decía avanzar en un nuevo modelo de inclusión laboral y social

y una mejora real de la situación de las personas más vulnerables ese es el objetivo señorías

y en ello tiene que poner todo su empeño creemos que en el país vasco podemos dar un paso estratégico claro en este sentido que el gobierno tiene que tomar una actitud clara de liderazgo y no caer en las autocomplacencias

que vivimos en una isla sino siendo muy conscientes de los retos y desafíos que tenemos en el futuro en un mundo globalizado y absolutamente interconectado avanzar en la defensa del estado de bienestar es asegurar su sostenibilidad y viabilidad dando respuesta precisamente a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad y desprotección y la política social debe de ser vista como una inversión social

de la manera más eficiente priorizando lo que hay que priorizar y no priorizando lo que no es prioritario y haciendo un reparto equilibrado de los recursos públicos para conseguir empleo la rentabilidad económica social y el fortalecimiento de las personas para acceder al mercado laboral y a la sociedad a través de un enfoque de ciclo de vida a continuación sí me gustaría hacer una breve referencia a las ideas que van a acompañar

repaso de todas las propuestas porque obviamente no tendría tampoco tiempo pero sí me gustaría hacer una breve referencia a las ideas que acompañan

creemos que es necesario que se recoja un plan que se articule un plan que recoja las medidas necesarias para hacer frente a la pobreza y a la exclusión social como ya ha solicitado este parlamento

plan especial que haga referencia a aquellos municipios y comarcas que tienen circunstancias especiales también hace falta

en medidas concretas que se encaminen a la prevención detección y atención a las situaciones de riesgo y exclusión social medidas específicas para prestar una

más vulnerables de nuestra sociedad también creemos que tiene que hacerse mayores esfuerzos en incrementar las medidas de coordinación con el resto de administraciones públicas implicadas implantar nuevos sistemas de detección de familias con menores en situación de riesgo

intervención y seguimiento concretos hay que también propiciar actuaciones encaminadas a las personas que han abandonado los estudios para que retomen formación hay que impulsar claramente la contratación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad

hay que incidir en colectivos como los jóvenes las mujeres los inmigrantes los parados de larga duración y las personas con discapacidad

incidir en la recolocación de aquellas personas que tienen más dificultades para acceder al mercado de trabajo

especialmente los mayores de cuarenta y cinco años con la puesta en marcha de medidas y actuaciones específicas hay que dar solución a las personas también que se encuentran en situaciones laborales de baja cualificación arbitrando las medidas

por ello también consideramos oportuno que es necesario elaborar un mapa de la empleabilidad en donde conozcamos también la distribución territorial de las distintas zonas en cuanto al desempleo se refiere en el empleo joven incidir en las medidas que faciliten el acceso a los jóvenes a un primer empleo a la formación y al aprendizaje profesional y el fomento también de vías alternativas como son el autoempleo y la puesta en marcha de proyectos

hay que promover y apoyar el emprendimiento y el autoempleo y a las empresas como motor fundamental regeneración de empleo en nuestra

a los jóvenes creemos que lanbide debe de empeñarse y debe de dirigir todos sus esfuerzos a esta tarea y que a día de hoy desgraciadamente no ofrece los resultados que la sociedad vasca espera de un servicio de estas características y sobre todo como decía con la oportunidad que daba la transferencia de las políticas activas de empleo y el conectar las prestaciones económicas previstas en la ley

hay que darles una oportunidad porque las personas que están en el sistema de protección y porque creemos en ello tienen que tener también una oportunidad porque el sistema no solo tiene que tener puerta de entrada

y por eso décimos que las actuaciones de lanbide deben de estar dirigidas prioritariamente al empleo en ese sentido también

articule las medidas necesarias para subsanar todas esas deficiencias hay que mejorar los resultados de la intermediación y ofrecer resultados eficaces en la intermediación

y las cifras que ofrece este gobierno en definitiva creemos que este gobierno tiene que tener un mayor liderazgo en relación a todas las políticas de inclusión en relación a la protección de las personas más desfavorecidas

más en situación de vulnerabilidad y creemos que puede hacerlo porque tiene medios para ello y tiene un instrumento fundamental como es lanbide servicio vasco de empleo

de una vez por todas y cumpla los cometidos en función de la ley tiene encomendados nada más y muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

egun on guztioi egun on lehendakari egun on sailburuok en euskadi no tenemos un problema tenemos miles de problemas los que están viviendo

que simplemente no pueden atender por sí mismas sus necesidades más elementales los que más nos preocupan a los socialistas vascos

social es la sexta parte de la población vasca y de ellas ciento trece mil en riesgo de exclusión severa es el último dato que nos ha sacudido

sobre lo que pasa hoy en euskadi y esto no afecta solo a esos miles de hogares y a quienes los habitan nos afecta a todos nosotros nos afecta como sociedad

debemos revisar todas las capacidades que ya tenemos todos los instrumentos en nuestras manos para decidir hacia dónde queremos llevar a euskadi

o con que los bancos hayan superado sus peores momentos

multimillónarias ayudas públicas y está bien

estén más saneados aunque seguimos echando en falta que favorezcan la actividad de las empresas y de las familias eso está bien pero no es que sea insuficiente

con el que se quiere distraer la vista de lo importante nuestro reto en este momento es recuperar a las personas a las familias y hacerlo recordando cuatro ideas fundamentales los vascos tienen derecho a un empleo y un sueldo que les permita vivir dignamente

a una sanidad y a una educación de calidad tienen derecho a una vivienda que puedan pagar los vascos tienen estos derechos y cuando las instituciones

ponemos en marcha instrumentos de solidaridad para ello contamos con instrumentos fiscales que nos permiten recaudar e instrumentos de redistribución de la riqueza

a su cargo y un presupuesto de más de diez mil millónes de euros para hacerlo y con ese dinero

las prioridades fijarse los objetivos y no ser meros notarios de la realidad batzuen ustez gaurkoa ez da eztabaida inportantea

ez ditugu orekak apurtzen dituzten diskurtso orokor onartzen y este tiene que ser nuestro punto

porque en ocasiones algunos de tanto ensalzar nuestro modelo de protección que no alcanza a todos y que aquí en euskadi en miles de hogares falta lo elemental y otros proclamarán su defensa del sistema público pasando por alto que han sido los promotores de ese descalabro social y pretenden esconder su responsabilidad enfrentando

los socialistas no queremos debates de reparto de las obras queremos un debate de derechos para todos los socialistas no queremos que se le pregunte a nadie por su origen

no queremos saber de dónde ha venido cada quién para hacer su vida en este país queremos saber si todos los que han decidido hacerlo tienen iguales oportunidades y derechos y hayan nacido donde hayan nacido hoy aquí hay pobres hoy somos menos iguales a la hora de satisfacer nuestro derecho a la atención sanitaria a una educación que corrija las desigualdades de origen a la justicia a las prestaciones por jubilación o a las ayudas sociales y lo cierto

en la defensa de los más débiles ha sido flojo usando nuestras competencias para compensar esta deriva y ahora vuelve a sacar de la chistera una ocurrencia sospechosa pues los socialistas nos reafirmamos

la educación pública y la protección social son sostenibles solo hay que dotarlas de recursos suficientes desde la justicia tributaria y la planificación estratégica

que los vascos tenemos en nuestras manos gracias al autogobierno además de con una adecuada gestión y adecuados controles la crisis ha incrementado hasta extremos insoportables la brecha de la desigualdad

esa brecha que se había estrechado durante décadas en españa gracias a las políticas de crecimiento y redistribución de los gobiernos socialistas esa brecha que habíamos estrechado aun más en euskadi gracias a los grandes consensos para levantar el sistema público

creemos que la lucha contra la pobreza y mantener las políticas sociales y empleos son instrumentos esenciales no solo para la cohesión y la solidaridad sino para seguir avanzando en igualdad y calidad de vida

es el sistema público lo que esta en peligro hoy esa brecha es la que sitúa a miles de conciudadanos

y a eso hay que dar soluciones inmediatas y estratégicas hace medio año en esta misma cámara hicimos un ejercicio

un ejercicio de compromiso con nuestro sistema sanitario público que fue respaldado en sus líneas estratégicas por el conjunto del parlamento debatimos y avalamos

lo planteó el actual gobierno que aprovechó las reflexiones estratégicas que había diseñado el ejecutivo socialista un primer ejercicio de responsabilidad

ha hecho con criterio ese plan de salud contempla un servicio sanitario justo equitativo y de calidad para todos y asume la sostenibilidad del sistema público

defendiéndolo desde principios de eficiencia y adopción de estrategias a medio plazo no de la exclusión de personas porque la exclusión del derecho a la salud conlleva costes sociales elevados y repercute en los sistemas

el propio plan define el sistema sanitario como una herramienta contra la desigualdad y explica la incidencia en la salud de la pérdida o limitaciones de esos derechos sociales mermados en esta crisis como la precariedad laboral o la vivienda los socialistas incluimos también

bizpahiru urte daramatelako lan aukera soil bat ikusi gabe y tener trabajo y tenerlo de calidad es más fácil con buena formación

reduce los costes del sistema sanitario permite disponer de una vivienda y reduce la necesidad de acudir a otro tipo de ayudas sociales

meter no en el bucle de excluir a nadie de la protección social lo que afecta a su salud le impide mejorar su formación limita la educación de sus hijos y le deja sin recursos para pagar su vivienda o las facturas de la luz los socialistas creemos que solo un empleo que garantice

puede hacer ciudadanos libres y hoy en dos mil catorce se está poniendo en peligro la capacidad protectora histórica del empleo según el eustat

que viven en hogares donde ninguno de sus miembros trabaja en el caso de las mujeres esa cifra se ha triplicado la tasa de paro de larga duración se ha multiplicado por diez

reforma laboral los despidos son más fáciles y esos puestos se cubren desde la precariedad vemos que el gobierno considera una tendencia positiva

en octubre porque prefieren compararlo con otros años no son mil doscientos ochenta y cinco personas que hoy tienen menos

que quieren trabajar y que no pueden son más que hace un mes y más que hace dos y todos y cada uno de ellos son una realidad

así lo debemos de atender y entender desde las instituciones salgan a la calle y digan

vayan a lanbide y díganlo allí no valen comparativas no valen tendencias positivas la tendencia de esas personas que se han incorporado a lanbide es negativa los socialistas no entendemos esos análisis positivos cuando todo conduce a que aumenta la pobreza y es así porque hoy la desesperación lleva a acceder a trabajos

son empleos de baja calidad con salarios ridículos que además apenas cotizan por lo que estas personas están condenadas en su futuro a pensiones mínimas

bajo el epígrafe del emprendimiento se están ocultando realidades de autoempleo de autónomos y de falsos autónomos sin derechos sin apoyos sin coberturas y también precarios

y la austeridad se está condenando a la pobreza a un sector importantísimo de esta sociedad

a la juventud no solo por que casi la mitad no encuentra empleo si no porque los que acceden a uno por esa precariedad no se emancipan y en las estadísticas aún no aparecen como personas en riesgo si no lo están hoy lo estarán en un futuro próximo conviene que en euskadi seamos conscientes de que esta realidad

y es mejor que ya hoy empecemos a poner remedio porque lo que está en juego es la base misma de la democracia y la dignidad del individuo empleo de calidad y de dignidad por la que están luchando hoy tantos trabajadores como antes otros

lo hacen los de condesa los de candy los de cablenor y mientras pelean por mantener sus puestos de trabajo se preguntan por qué los inversores se van

en nada para ellos empleo de calidad y de dignidad por la que los profesionales sanitarios han salido a la calle en movilizaciones desconocidas

y se preguntan por qué su gobierno no planifica plantillas estables que necesita para prestar este servicio público a los ciudadanos empleo de calidad y dignidad por los que los trabajadores de radio euskadi silencian la radio pública durante una semana después de haber dado un toque de atención inédito en junio y sin que su gobierno diga media palabra por un ere encubierto en una empresa pública

va a dejar en el limbo legal a los cientos de personas que se han preparado para acceder a un puesto de trabajo cuántos trabajadores en euskadi peleando por sus empleos y su dignidad mientras ven a su gobierno presentando planes y programas que ellos

e inseguridad nuestras propuestas de resolución irán así dirigidas además de a asentar los principios a abordar cuestiones inmediatas

podemos resolver en la propia tramitación de los presupuestos propuestas para incentivar el empleo y la formación para propiciar desde las instituciones que ese empleo sea de calidad para que reforzar mediante el empleo público la calidad de nuestros servicios esenciales para atender las emergencias hogares pero también para empezar a poner piedras para el futuro para salir de esta crisis atajando la desigualdad brutal que se ha instalado también en euskadi con menor intensidad cierto pero igual de brutal para cada familia que lo está pasando mal y a la que no le consuela ningún dato económico

los socialistas queremos tener como cifras de referencia para nuestra acción política las que nos ponen todos los días sobre la mesa quienes más pegados están en la calle

además de con los partidos políticos de esta cámara y con los sindicatos he mantenido encuentros con gran parte de esas organizaciones pegadas a la calle

con sareen sarea y con ekain que agrupa a doscientos asociaciones encargadas

sociales junto con compañeros de mi ejecutiva hemos compartido diagnósticos hemos preparado esta sesión y hemos incluido sus aportaciones hoy están aquí y quiero agradecerles expresamente su trabajo y su disposición para colaborar en que

consigamos ofrecer consensos sólidos y respuestas a tantas preguntas en estas reuniones hemos constatado que en euskadi nuestra red de protección que algunos cuestionan ha sido el colchón que ha permitido que hoy nuestra pobreza infantil o nuestra tasa de paro sea inferior a la del resto de españa pero

que hay aquí en euskadi nos ha contado cáritas como

y que muchas de ellas están en situación límite que viven gracias a la pensión del abuelo o que no se pueden permitir el mínimo gasto que no sea ordinario

intermón y lo han expuesto en su último informe que en esta crisis el dinero

ha cambiado de manos que los tres españoles más ricos tienen ahora el doble de recursos que la quinta parte de la población española lo que nos hace insistir en la necesidad de seguir buscando recursos que los hay a través de la fiscalidad y especialmente

del sistema son datos que se añaden a los que nos trajo en julio

en riesgo de pobreza y la mitad de hogares con dificultades sin esperanza ni derecho a una infancia feliz como nos recuerdo unicef

sobre una juventud que no puede emprender un proyecto de vida y cree que va vivir peor que sus padres

la red europea contra la pobreza también nos ha dicho en su informe más reciente que invertir en lo social nos ha salido a cuenta a todos los vascos

nos ha hecho crecer a todos nos ha demostrado que el dinero de todos empleado

y que además de haber evitado ese número de parados en lanbide ha impedido que nuestra riqueza global

y estos colectivos nos dicen también que si actuamos contra el subempleo y si atendemos los demás derechos sociales no solo hablaremos de un subsidio para atender necesidades sino que estaremos limitando la exclusión guzti hau gizarte zerbitzuen

alegia indartu y planteamos que el gobierno

la creación de un fondo interinstitucional para la cohesión y calidad del sistema vasco de servicios sociales y de inclusión ya sabemos que nuestra sociedad se encamina al envejecimiento sabemos que va a haber nuevas necesidades de atención a los mayores

empecemos a afrontarlo con apuestas definidas por eso proponemos este fondo de cohesión de carácter temporal y destinado a actividades concretas y muy definidas

para el diseño y pilotaje de programas y sistemas más eficientes y satisfactorios de intervención social

aptas para el desarrollo de modelos de prestación de servicios sociales más domiciliarios y comunitarios con especial atención a los servicios de teleasistencia

ahorros constatables en las políticas sanitarias y de garantía de ingresos programas piloto para el desarrollo de servicios sociales virtuales domiciliarios y comunitarios que potencien el aprovechamiento y transformación de las viviendas en euskadi y la coordinación entre la política de servicios sociales y la política de vivienda

del tejido comunitario y las organizaciones solidarias del tercer sector social de euskadi que intervienen en el sector de los servicios sociales tenemos que superar el debate de las ayudas y sus beneficiarios y afrontar ya la consolidación del sistema de bienestar no improvisar nuevas tasas para pagar la atención a los dependientes lo que falta en lugar de lanzar globos sonda

desarrollar las de la renta de garantía de ingresos y lanbide y definir con concreción la carta de derechos sociales ez ditugu gastu berriak proposatzen

es inversión según un estudio del profesor zubiri las políticas sociales tienen un efecto

porque se traducen en rentas que se consumen en el propio territorio el efecto que tiene ese gasto en servicios sociales es ya un treinta por ciento superior al sector servicios un sesenta por ciento superior a los de la construcción la agricultura y la pesca y duplica a los de la industria esto en cuanto a su efecto en gasto pero es que además

empleados en servicios sociales vuelven a las arcas públicas a través de impuestos y cotizaciones y tiene un impacto directo en el empleo en cualquier otra actividad

invertidos se crean unos diecisiete empleos más o menos en este caso en los servicios sociales se crean veinticinco empleos conocemos ya

ha tenido en reducir la pobreza y mejorar la riqueza general tenemos claro que vamos a necesitar más servicios sociales para atender la demanda de una sociedad envejecida contamos con organizaciones del tercer sector que conocen el terreno en la calle y están dispuestas a invertir y contratar si cuentan con el apoyo de las instituciones

comencemos ya a definirlo impulsemos ese fondo definamos sus objetivos y volvamos a poner a euskadi a la cabeza de la innovación desarrollo y cohesión social

las que han permitido en diferentes momentos de nuestra historia abordar con éxito diferentes realidades sectoriales y de país

permite superar viejas políticas que por inercia institucional siguen consumiendo fondos sin ofrecer el necesario impacto social

los socialistas hemos venido a este pleno con la voluntad de renovar un pacto social

un pacto que involucre a todos y cada uno de los vascos que todos los ciudadanos de este país sientan como suyo lo que es suyo un sistema de cohesión social que garantiza los derechos de todos sin exclusiones y que se debe de mejorar aún más eficaz ante los retos de futuro es lo mejor que hemos sabido hacer desde que tenemos competencias para obtener recursos y competencias para distribuir esos recursos y todos y cada uno de nosotros en este parlamento y fuera de él

activamente en su defensa y mejora porque el futuro de euskadi nos lo jugamos en todo esto de lo que estamos hablando hoy de renovar ese modelo o de dejarlo desvanecerse

decente por eso creemos que no debemos conformarnos con sacar adelante un puñado de resoluciones unas con unos votos y otras con otros votos de este debate debemos salir ganando todos definiendo con claridad el punto de partida

y los ejes sobre los que actuar y en los que con las aportaciones y matices de cada cual debemos empeñar nuestros esfuerzos planteamos renovar un contrato social que tenga la corresponsabilidad como elemento integrador del nuevo modelo sostenible de país tenemos una sanidad y una educación que tiene que seguir siendo el pilar fundamental para salir de la crisis y un sistema de pensiones

tenemos una buena base de políticas de protección social tenemos una economía que ha generado riqueza y bienestar para todos los socialistas estamos convencidos de que todo esto

asumimos compromisos individuales y compromisos colectivos un contrato en el que definimos qué es lo que cada uno debe aportar a la comunidad

deben garantizar a cada individuo no trasladamos una idea nueva está planteada ya en este parlamento hace cuatro años por el gobierno socialista del que formé parte no se pudo consolidar porque no se quiso entender entonces la importancia de contar con más recursos

o en formación empleo y formación que a su vez permiten seguir obteniendo recursos

ese bucle porque contar con un empleo que permita disponer de un sueldo con el que satisfacer las necesidades elementales junto con la garantía de los servicios públicos es para impedir la brecha de la desigualdad pero nunca es tarde hoy queremos volver a llamar a la corresponsabilidad corresponsabilidad entre empresarios y trabajadores para crear riqueza y puestos de trabajo

de calidad y que podamos pagar corresponsabilidad entre la población activa y las personas que no pueden acceder al mercado laboral corresponsabilidad de los que reciben prestaciones sociales con su propio futuro y queremos llamar a la responsabilidad nuestra a la que tenemos en este parlamento tenemos en este parlamento y en todas las demás instituciones de euskadi a nosotros nos corresponde buscar soluciones y no crear problemas nos corresponde buscar la mayor eficacia de nuestra administración y de nuestros recursos sociales debemos exigir buena gestión

nos corresponde implicar a los ciudadanos en ese sentido del bien público puesta en valor y buen uso del mismo y nos corresponde hacer una evaluación permanente

fijarnos plazos objetivos y analizar de forma periódica si han sido útiles y nos corresponde también seguir apostando por la educación y el desarrollo como motor también de nuestro crecimiento económico competitividad y creación de empleo eskubiderik gabeko lan kontratuak

hablaron de ciento cincuenta propuestas que van desde el empleo privado y público la vivienda políticas sociales fiscalidad salud soberanía alimentaria ganadería agricultura pesca educación energía

el empleo y la reactivación económica para euzko abertzaleak las personas todas las personas son el eje que centran nuestras políticas y en este sentido

en la que las personas puedan desarrollarse trabajar y ganarse la vida dignamente entendemos el empleo como un factor fundamental para la participación

estamos convencidos del efecto integrador que tiene el empleo su importancia para luchar contra la exclusión social y la pobreza el programa electoral

así como los discursos de política general han tenido presente la necesidad de reactivar la económica de establecer los mimbres

porque está claro que el empleo no se crea por decreto si fuera tan fácil por eso el gobierno vasco está trabajando desde el principio insisto de legislatura

por la larga crisis que venimos padeciendo la respuesta del gobierno a los compromisos con el empleo y la reactivación económica se basan en el plan de empleo

se centra a su vez en seis pilares fundamentales que desgranaremos más adelante con medidas concretas en cada apartado

para las distintas acciones contempladas bajo cada epígrafe

del plan de empleo dos mil catorce dos mil dieciséis a pesar de que varias de las acciones se iniciaron previamente en dos mil trece que han sido vinculadas

gelditzea batipat respeto al plan de empleo recordar los seis ejes

empleo juvenil garantía joven cuatro formación para el empleo cinco inserción laboral solidaridad por el empleo programa renove rehabilitación aspectos que todos los portavoces que me ha precedido en el uso de la palabra han mencionado en sus exposiciones

apoyo a la economía y desarrollo local basado en tres ámbitos principales comercio y turismo y desarrollo rural y litoral para mantener el empleo respeto a la financiación de pymes y autónomos que ha sido recurrente reconociendo la labor de este colectivo

de la actividad económica de euskadi se han desarrollado iniciativas específicas dirigidas a este colectivo para reducir y financiar los proyectos de inversión productiva así como un programa especifico de avales y microcréditos en colaboración con distintas entidades financieras

en cuanto al desarrollo del turismo y el comercio local se han tomado medidas que van desde la modernización de equipamientos comerciales e incorporación de las tics en el comercio hasta ayudas para la mejora de empresas turísticas y para la competitividad turística

se han tomado medidas en el desarrollo del sector primario con la puesta en marca de distintos

al sector agrario vasco formación para el empleo también en este sector o

del plan de empleo fomento del emprendimiento para recuperar nuestra tradición emprendedora y haciendo especial hincapié en la potenciación

y microemprendimiento y las nuevas empresas innovadoras se está apoyando desde administración el fomento de la actividad cultura

desde los primeros niveles hasta la formación profesional y la universidad y no necesaria y exclusivamente unido a la época de crisis sino siempre

que sirvan para atraer personas investigadoras de la comunidad científica internacional y para que nuestros y nuestras jóvenes se puedan quedar a trabajar en los polos de conocimiento con autentica proyección

tercer eje empleo juvenil garantía joven es imprescindible fomentar la empleabilidad y la inserción juvenil para ello la labor del gobierno se apoya en cuatro ejes

la tasa de desempleo juvenil es preocupante por eso desde el gobierno se están impulsando medidas que favorecen el autoempleo el emprendimiento juvenil

en sectores emergentes y programas de primera experiencia laboral me gustaría detenerme en el programa lehen aukera por su importancia y porque ha sido positivamente

varias de las propuestas alegadas por los y las jóvenes que han mejorado sustancialmente el programa desde su puesta en marcha cuarto eje del plan de empleo formación

para favorecer el empleo tanto de las personas desempleadas como de las personas ocupadas la inversión en formación es inversión de futuro

y la principal garantía de empleabilidad de las personas trabajadoras es necesario fomentar el aprendizaje durante toda la vida laboral para lo cual el parlamento

quinto eje inserción laboral solidaridad por el empleo

planes locales y comarcales de empleo con actuaciones especificas dirigidas a planes de desarrollo rural incentivos a la contratación y capacitación e inserción de personas

para colectivos desfavorecidos centros especiales de empleo empresas de inserción ayudas a la contratación indefinida de personas con discapacidad en empresas ordinarias sexto eje renove rehabilitación apoyando programas de rehabilitación de lo construido

habida cuenta que el sector de la construcción ha sido uno de los que más han sufrido los efectos de la crisis desde el gobierno se quiere impulsar la rehabilitación tanto de viviendas

y que los edificios sean energéticamente más eficientes así como la regeneración de ámbitos urbanos degradados como decíamos

el otro documento fundamental en el que se basa la política del gobierno desde el inicio para generar actividad económica y empleo es el plan de reactivación económica

de la consejera arantza tapia estos cuatro

innovación internazionalización e industrialización el compromiso con la reactivación supone impulsar nuestra economía nuestras empresas lograr que sean más competitivas

primaremos la eficiencia el ahorro energético y la internacionalización

clave de competitividad inversión el gobierno como dinamizador de la inversión pública para la creación de empleo en todo tipo de infraestructuras

segundo innovación reinventarnos para seguir compitiendo con cinco ejes prioritarios investigación científica y universitaria plan universitario

de proyectos tractores agentes científicos y tecnológicos y transferencia del conocimiento e innovación a las pymes tercero investigación agroalimentaria cuarto investigación social ciencias de la salud medioambientales innovación social

ikerbasque becas de investigación innobasque tercer eje internacionalización orientación exterior clave tanto para nuestras empresas como para nuestro país

la internacionalización institucional basada en tres aspectos estrategia de país acción exterior

multisectorial e internacionalización empresarial impulsando a empresa vascas multilocalizadas

de pymes y capital humano en la internacionalización por medio tanto de becas como de prácticas en el exterior cuarto eje industrialización

industrial mediante los siguientes programas gestión de recursos y competitividad

y emprendimiento con sus correspondientes ejes de apoyo a la financiación y reestructuración de pymes apoyo a la inversión e impulso a proyectos estratégicos y un último programa de desarrollo energético y minero con un eje para generar un contexto

podemos decir sin miedo a equivocarnos y con toda la prudencia que la situación requiere que los planes puestos en marcha por el gobierno

pequeños si se quiere pero no olvidemos que la estrategia está marcada para el período dos mil catorce dos mil dieciséis por lo que continuaremos avanzando no les quepa la menor duda

desarrollo de turismo local azken udako datuak benetan onak izan dira turismoari dagokionez el verano de dos mil catorce ha sido el mejor de la historia gracias a un crecimiento del ocho coma ocho por ciento con respecto a los datos de hace cuatro años además el cuarenta y cuatro por ciento de estos turistas han sido extranjeros los visitantes han superado a los que llegaron a la comunidad autónoma en dos mil doce cuando se registró el último récord

laboral solidaridad por el empleo se pusieron en marcha sí con cierto retraso los planes locales y comarcales de empleo que han servido para contratar por los ayuntamientos y entidades locales a personas que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad y dificultad de acceso al empleo personas beneficiarias de rgi

de larga duración renove rehabilitación el impulso a la rehabilitación de viviendas edificios y barrios degradados también ha tenido sus consecuencias positivas puesto que según los datos de la epa uno de los sectores donde más

respecto a los resultados del plan de reactivación económica decir que el sector industrial sigue siendo la base de la economía vasca

decisiva a alcanzar el nivel de vida más elevado del estado y que mantiene a euskadi como la comunidad autónoma con mayor renta per cápita

de mercado tan solo una décima menos que en dos mil ocho algo habrán tenido que ver en estas cifras las políticas que desde el gobierno se están implantando para favorecer el mantenimiento de la industria

asimismo la apuesta por la internacionalización también está obteniendo sus frutos ha sido líder en mayor en el crecimiento de exportaciones en el estado y también podemos atribuir parte del éxito de la temporada estival en cuanto a batir el récord de visitantes en periodo estival a la estrategia basque country puesta en marcha por el gobierno estos datos

aunque con cierta prudencia las acciones emprendidas por el gobierno están dando sus frutos se está reactivando la economía gracias en parte también

desde el inicio hemos venido insistiendo en la necesidad de crear las condiciones

las políticas puestas en marcha por el gobierno empiezan a revelar datos positivos e incluso se ha empezado a crear empleo neto en el tercer trimestre del dos mil catorce

el empleo es un factor fundamental para la participación integración e inserción plena en la sociedad estamos convencidos
del efecto integrador que tiene el empleo y de su importancia y aunque se ha empezado a generar empleo neto amaia barkatu mesedez kenduko dituzue kartel horiek

mesedez kenduko dituzue kartel hori por favor retire el cartel
y aunque se ha empezado a generar empleo neto la persistencia de la crisis y la consiguiente destrucción de empleo se está dejando notar habiendo aumentado la vulnerabilidad de muchas personas en euskadi tenemos un sistema de protección social pionero comparable a los países más desarrollados de europa las ayudas contempladas en la ley sobre todo la rgi y la pcv

fuera de los umbrales de pobreza y de la marginación estas ayudas instauradas hace veinticinco años han sido y deben continuar siendo

por ello aprobamos con amplia mayoría en el parlamento la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social

subsistir dignamente euzko abertzaleak tiene clarísimo la necesidad de mantener el actual sistema de protección social ahora bien creemos que es necesario imprescindible me atrevería a decir un gran pacto social acordar entre todos partidos políticos grupos parlamentarios diferentes niveles institucionales

la sostenibilidad y viabilidad del sistema porque creemos que un universo sostenible como decía esta misma semana el consejero aburto exige límites en el hoy para que nuestros hijos e hijas puedan desarrollar similares fines en el mañana porque son personas que deberán tener acceso a los mismos derechos que hoy gozamos nosotros o al menos ese debe ser nuestro ideal la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social

la que permite vivir dignamente a muchas familias y personas a continuación mencionaré varias ideas que he recogido de la declaración institucional del ararteko

para la erradicación de la pobreza que hacemos nuestras en euskadi existen familias en situación de pobreza y hay muchas familias en riesgo de exclusión social

euskadi dispone de una red de protección social que si bien no cubre la totalidad de las necesidades existentes produce el efecto de situar en niveles inferiores a la media europea los índices de pobreza el dispositivo más importante de la citada red de protección social

esta prestación de contenido económico ha cumplido veinticinco años y hasta la crisis

consenso político y social que permitía que la gestión de esta prestación estuviese exenta de conflictividad y polémica askotan esan dugu

aurkako eraso larria litzateke la segunda parte del lema de naciones unidas pensar decidir y actuar juntos contra la pobreza todas las instituciones y administraciones

hay que pensar decidir y actuar juntos trabajar por reforzar los consensos políticos y sociales que han sostenido durante la mayor parte de su existencia

que el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión social se mantiene y cumple debidamente y ha de procurar la mejora de la eficacia

cubriendo las necesidades asociadas a la vida digna de todas y cada una de las personas que viven en euskadi

estamos convencidos que el sistema funciona y que debe seguir funcionando para las siguientes generaciones

es necesario sentarnos hablar y acordar para mejorar la tramitación

a mantenerse en niveles inferiores de pobreza que la media europea cuando se aprobó hace veinticinco años la rgi el señor josé ignacio arrieta

el consejero escribió en euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece sino de la sociedad y como tal su solución no puede ser patrimonio de nadie sino de responsabilidad de todos apelamos

y de responsabilidad de todos y todas para continuar por esa senda del acuerdo para que el sistema continúe mejorado su existencia durante otros veinticinco años más como mínimo es cierto que la crisis ha empeorado la situación de muchas personas

se hayan incrementado las personas que se encuentren en riesgo de pobreza real o están en situación de ausencia de bienestar tal y como se desprende de los datos de la encuesta de pobreza y desigualdad del año dos mil dos

el sistema que tenemos que ha permitido y continúa permitiendo a muchas personas mantenerse fuera de los índices de pobreza

hagámoslo conjuntamente y reconozcamos que el gobierno está trabajando en la generación de empleo se está generando empleo neto y en la radicación de la pobreza los datos así lo avalan ojalá

el gobierno continúa trabajando en este sentido tomando medidas al respecto

y el consenso de todos y todas un debate sosegado y razonable que nos permita continuar siendo lideres en protección social tanto en el estado